sorburu dutela botere harremanetan eta emakumeen menderatzeko harremanetan el parlamento vasco invita a la ciudadanía

asimismo insta a las instituciones que tenemos una responsabilidad crucial en su erradicación

para lograr su definitiva desaparición de tal modo que no se vuelva a producir ningún acto de violencia contra las mujeres y mucho menos asesinatos como los que costaron la vida a

preguntarán por qué un grupo como el nuestro

colectivo de técnicos y técnicas de medioambiente habida cuenta de que son un colectivo relativamente minoritario

y que es una cuestión que no ha tenido ninguna repercusión mediática hasta la fecha sin embargo nos ha parecido una cuestión importante para traer a pleno porque

es muy definitoria de dos cuestiones importantes que afectan

creemos que es reflejo de la situación en la que se encuentra la función pública en euskadi y

por la situación de los trabajadores y trabajadoras de la administración general sino de todas las instituciones vascas la función pública en euskadi está olvidada sin recursos materiales sin el reconocimiento público que necesitarían los trabajadores y trabajadoras que

desmantelada después de recortes de sueldos y de personal y sin el remplazo generacional que necesitarían para

pues bien los técnicos y técnicas de medio ambiente se encuentran aún peor soportan unas tasas de interinidad del setenta por ciento mientras que la administración general tiene una media del treinta

y hay personas que las ocupan desde hace más de veinte años y que por pertenecer a cuerpos minoritarios con titulaciones minoritarias no han tenido en estos veinte años ni siquiera la posibilidad de someterse a un proceso público de empleo por otra parte

al gobierno de turno correspondiente a ahora desde hace muchos años muchas legislaturas oímos discursos vacíos sobre sostenibilidad y la aprobación de leyes en este mismo parlamento para las que luego no hay dinero para hacerlas cumplir

proposición no de ley que por suerte hemos sido capaces de transaccionar con la mayor parte de los grupos de esta cámara es una buena oportunidad para revertir esta situación no solamente la

el gobierno tiene la posibilidad de poner en marcha medidas que reviertan esta situación como digo

urge valorar a los y las trabajadoras públicos reduciendo la interinidad y consolidando las plantillas es necesario

que después de años y años de trabajo pueden quedarse en la calle en cualquier proceso público de empleo y por otro lado es preciso evitar el despilfarro de los recursos

que en un momento dado debido a procesos internos se puede quedar en la calle en segundo lugar preciso conseguir que la función pública el personal técnico tenga la experiencia y la formación adecuadas y esto es lo que nos sucede con los técnicos y técnicas de medio ambiente como he dicho

donde pueden entrar hasta veintisiete titulaciones diferentes sin ningún tipo de experiencia y eso les pone al albur de que cualquier proceso selectivo deje en la calle a personas

y que puedan entrar personas que sin negarles la valía les falten esos conocimientos y esa experiencia de ahí que en nuestra proposición no de ley se reclamase la creación en la escala de técnicos y técnicas de medio ambiente que solucionase

y esto no es algo que pide solamente elkarrekin podemos allá por el mes de junio creo que fue en el mes de junio aclima que es el clúster de empresas

un comunicado en el cual decía expresamente decía son necesarias medidas que aseguren una especialización imprescindible para ofrecer un servicio de calidad

y decían además la inexistencia de la categoría de técnico en medioambiente da lugar a que las personas que se incorporan vengan sin el conocimiento del área

junto a la creación de la escala otra cuestión importante es que este gobierno que este país

suficientes me refiero no solamente a recursos materiales sino también económicos

no solamente se trata de incrementar las plantillas de la administración pero también por qué incrementar las plantillas bueno pues vuelvo a ceñirme a lo que dice aclima

de esta cuestión el empresariado de este sector donde dice la reducción del control ambiental

por parte de operadores privados generalmente habituados a funcionar fuera del sistema o cito textualmente más coloquialmente hablado piratas del sistema es decir

lo que provoca es que en última instancia quien lo hace bien esté

tenga una competencia desleal por parte de quien lo hace mal pero al no haber plantilla suficiente

contra esas entidades o esas personas o esas empresas que lo hacen mal pero además

y dice aclima que es habitual para el sector privado disponer de plazos de respuesta de más de dos años en procedimientos de nuevas autorizaciones ambientales tengo que recordar a este gobierno que hace muchos esfuerzos en muchos ámbitos para reducir las cargas administrativas para reducir los plazos administrativos y sin embargo tenemos una simple falta de personal en las autorizaciones ambientales que son requisito imprescindible para cualquier nueva actividad económica que se desarrolla en el país

y dicen además que más de un año en el procedimiento ordinario de calidad del suelo

anteriormente por la mañana a la cuestión de la necesidad de recursos no solamente económicos sino también de personal en fin que entendemos que destinar los recursos suficientes a la protección del medio ambiente es apostar no solamente

más prospera más moderna y más sostenible por lo tanto

pero y aprovecho aquí para pedir al gobierno que amplíe este consenso para un colectivo limitado de sesenta personas a todo el personal de la administración general

del personal de la administración y entendemos desde elkarrekin podemos que una sociedad democrática que una sociedad avanzada necesita de una administración sólida estable
útil y valorada por la ciudadanía nada más mila esker eskerrik asko becerra jauna

gracias señora presidenta señor lehendakari consejeros señorías buenas tardes a todos

el señor becerra en nombre del grupo elkarrekin podemos porque entendemos que trata de poner solución a un problema que ya estaba encima de la mesa antes de la llegada del verano

desde hace años pero a nosotros se nos ha trasladado recientemente cuando a los trabajadores de este departamento de medio ambiente los empleados públicos pusieron en conocimiento de todos los grupos cuál era su situación y cuáles eran los efectos del vigente

los efectos que podía tener sobre la situación personal de cada uno de ellos en el desempeño de sus funciones en los puestos de los que no son titulares y sobre todo en el devenir diario del trabajo del departamento ante esa situación se solicitó la comparecencia tanto de la viceconsejera de medio ambiente la señora moreno como del señor zearreta

nos explicaron el punto de vista sobre este asunto que tenían los dos la señora moreno la viceconsejera de medio ambiente circunscribió el problema

este departamento treinta y nueve trabajadores no son muchos lógicamente dentro del volumen

pero el desempeño de sus funciones sí es muy importante porque todas las políticas medioambientales todos los informes técnicos pasan pasan por sus manos ella nos expresó

no grata bastante ingrata sorpresa al ver el grado de interinidad que superaba a la media casi en el doble es decir pasaba de algo más del treinta por ciento que tiene la función pública en euskadi hasta casi el setenta por ciento dentro de ese pequeño

puesto que no habían entrado en la ope del año dos mil estaban ahora dentro del concurso de traslados y podían perder su puesto de trabajo puesto que son muchas las titulaciones con las que se puede acceder a esos puestos concretos puesto que sus perfiles son excesivamente abiertos y no está creada un a escala concreta dentro de la normativa que permita

de hacer o de tramitar esos expedientes que es muy necesaria para el gobierno vasco

ella nos dijo que se le había trasladado a función pública pero que había observado que lógicamente

que hacía que los expedientes se llegarán a ralentizar e incluso duplicar

cientos miles de personas que directamente han iniciado expedientes ante ese departamento o que han iniciado en esta o en otras instituciones expedientes autorizaciones licencias etcétera etcétera

cuya tramitación son necesarios y preceptivos los informes de medio ambiente y que precisamente

claro eso tiene un efecto muy grave respecto de esas personas o de esas empresas que inician esos expedientes sobre la salud medioambiental de todos los ciudadanos de la comunidad autónoma y nuestros vecinos y en general sobre la actividad económica aquí es donde ella hizo saltar todas las alarmas pero parece ser que esas alarmas

puesto que cuando el viceconsejero nos dio las explicaciones de por qué

y desde hacía mucho tiempo no se había hecho nada puesto que el de hecho ya ocupaba la misma o

anterior aunque la situación insisto no se puede culpar a este gobierno puesto que viene de gobiernos o de épocas anteriores incluso más atrás del dos mil diez

en el concurso de traslados se habían negociado con los sindicatos y que todo lo que no pasa por la mesa de negociación no puede llevarse a cabo y que por lo tanto estos

sorprende mucho esta afirmación de alguien que nos presentaba a finales de la legislatura pasada

nuevo que no tenía el acuerdo de ninguno de los sindicatos es decir la excusa de los sindicatos vale para algunas cosas y para otras no y en esta

de los oídos taponados que tienen en ese departamento de cara a la mesa general de la negociación por lo tanto

de solución de momento sino que efectivamente el concurso de traslados que ya está en marcha iba a afectar de lleno a esos treinta y nueve puestos del departamento de medio ambiente

la iniciativa para que podamos buscar una solución y como todas las soluciones que van acordadas por todos o la mayoría de los grupos de esta cámara al final tienen que ser más o menos amplias para que todos los grupos puedan entrar al acuerdo

a obtener hoy el respaldo de la totalidad de la cámara lleva tres puntos el primero de ellos insta al gobierno a que dentro del marco del plan de empleo público vasco que está vigente que está en marcha se analice cuál es la situación de esos funcionario del departamento de medio ambiente cuáles son sus necesidades

que es fácil que lo aprobemos hoy porque ya está hecho porque ya los dos viceconsejeros nos han dicho cuáles son los problemas creen que debieran ser las soluciones el segundo punto del acuerdo habla de que cuando se traiga a esta cámara y la aprobemos entre todos esperemos que los antes posible la nueva ley de empleo público vasco

blindar o estabilizar de alguna manera las plantillas aquellos trabajadores públicos que

para el desarrollo de la actividad diaria de la administración y que no se puede dilapidar por un simple concurso de traslados o un problema de movilidad de los funcionarios y por último el último punto que es el que a mí me parece más importante insta al gobierno a que en el plazo de un año

un proyecto de ley que reforme la ley del año dos mil cuatro la ley de cuerpos y escalas de la administración general de la comunidad autónoma vasca y sus organismos autónomos en el que se cree específicamente esta plaza de los técnicos de medio ambiente nosotros lógicamente y así lo hemos manifestado y lo hemos firmado estamos conformes con estas tres posiciones y vamos a aprobar hoy la moción pero no me gustaría terminar la intervención

sin añadir una posibilidad este es un acuerdo de mínimos yo exhorto al gobierno

de la misma manera que ese proyecto de ley de cuerpos y escalas tardará lo que tiene que tardar hasta que nos llegue aquí y este es un problema que tenemos

en la actividad medio ambiental y en nuestra actividad económica se pueden buscar soluciones más rápidas ya se hizo en la legislatura pasada se hizo con la ley de emergencias del dos mil dieciséis había una disposición final que creaba una escala específica

y escalas del año dos mil cuatro una modificación puntual en cualquier proyecto normativo que se esté tramitando que con la ley de los presupuestos daría una solución inmediata y sería un primer paso

afectados del departamento de medio ambiente que no han tenido el respaldo de ningún grupo sindical que habría llevado sus peticiones a una mesa de negociación

puede tener muy graves consecuencias para toda la actividad de la administración en general y de muchos ciudadanos y sobre todo de nuestra actividad económica por esos retrasos
que son ilegalidades en la actividad en la resolución de los informes y de las solicitudes que se presentan muchas gracias eskerrik asko

proposición no de ley que parte del conocimiento concreto de la situación en la que se encuentra el personal de una de las áreas del gobierno vasco en este caso la adscrita al departamento de medio ambiente los socialistas ya arrastrábamos esta preocupación en la pasada legislatura y esta se acrecentó

y adaptarlas al reto que tenemos que es el reto del cambio climático

y que deben de tener reconocida su competencia y capacidad para volcarse en las tareas que nos hemos puesto por delante en esta legislatura

sino que es un mal que afecta a todas las áreas del gobierno porque tal y como reconoció el viceconsejero de función pública en la comparecencia que realizó en comisión el pasado treinta de junio uno de los problemas que les acosan es la alta tasa de interinidad en la administración general del país vasco y que situó en un entorno del cuarenta y seis por ciento un dato que también es cierto ya se ha dicho no es nuevo y que ha propiciado el debate

los socialistas junto con el resto de los grupos compartimos que el objetivo que debemos de perseguir es el de una administración eficaz que preste servicios de calidad

un proceso en el que resulta imprescindible bajo nuestro punto de vista que el trabajador público se sienta participe necesitamos una mejora continua de la gestión administrativa

con diversas herramientas que no solamente pasan por los recursos de persona sino que también van desde la simplificación de procedimientos como se nos contó también en esa comisión por la viceconsejera

en la formación o en la capitalización del conocimiento

se ha dicho de forma previa en esta tribuna ya se ha realizado y los datos están perfectamente reflejados en el plan de empleo que hace más de dos años se presentó

con una media de cincuenta y uno años con una alta tasa de interinidad y que se jubilará muy mayoritariamente en un plazo inferior a doce años los objetivos

rejuvenecer la plantilla consolidar los puestos de interinos para evitar la descapitalización del conocimiento alcanzar la igualdad de género

las nuevas necesidades pero para ello para que esto pueda hacerse es fundamental

de las personas interinas que trabajan desde hace años en la administración porque es un lujo que no nos podemos permitir porque la administración no se puede permitir perder el conocimiento y las destrezas adquiridas por estos trabajadores a lo largo de los años porque ello incidiría sin duda alguna

y eso también se reconoció por ambos viceconsejeros en la comisión en la que comparecieron y todo esto tiene su reflejo en el departamento de medio ambiente que es el que ha dado lugar a este

una repercusión importante fundamentalmente por la materia en la que trabajan con una tasa de interinidad muy superior a la media de la administración general y con unos puestos que requieren de unos conocimientos muy especializados máxime si se tiene en cuenta la legislación vigente legislación

o de la propia comunidad y la complejidad técnica de la misma esto nos lo trasladaron los propios técnicos del departamento que se dirigieron a los grupos parlamentarios

así como de recursos invertidos en su formación y este axioma no lo puede negar nadie no lo niega ninguno de los grupos pero tampoco lo niega nadie del gobierno este personal

lleva dando muchos años un solvente respaldo técnico a decisiones de gran calado medioambiental dada la acumulación que tienen

en evaluación medioambiental en imposición de medidas correctoras o en la propia inspección de industrias por eso

que en este momento el gobierno está negociando cómo mantener el capital humano para que ese conocimiento el de todos los departamentos se quede y siga manteniéndose en la administración y esperamos y lo deseamos aún a pesar de que no haya habido ese encuentro este martes

en los que siempre será mejor alcanzarlos que quedarnos en posturas maximalistas porque la administración para que sea eficiente y eficaz y pueda prestar

del gobierno pero también de aquellos que tienen que negociar con el gobierno para poder llegar a poner en marcha determinados instrumentos y yo también he de reconocer que cuando se conoce el diagnóstico que cuando se comparte los objetivos y cuando se conocen cuáles son las herramientas que se pueden utilizar pues es más fácil poder llegar a acuerdo y esto lo que va a suceder hoy con esta proposición no de ley en la que cuatro grupos

la va a apoyar por tanto saldrá por unanimidad entonces hoy el

de los grupos que dentro del plan marco de empleo dentro de ese marco el gobierno analice las necesidades de personal de la viceconsejería de medio ambiente que se nos expusieron

pero que también han sido ya remitidos por la propia viceconsejería

respalda esa petición que se está haciendo desde la viceconsejería para que el departamento en función pública en segundo lugar instaremos también a que el gobierno establezca las previsiones necesarias para acometer un proceso de estabilización de plantilla a través de la convocatoria de procesos de consolidación

trabajadores interinos y entre ellos les suscribimos que tenga muy en cuenta a los adscritos al departamento de medioambiente y por último hemos acordado pedir al gobierno en un plazo esta mañana se decía también en alguna proposición no de ley que se trabajaba que es importante poner plazos

se pone el plazo el plazo de un año para modificar la ley de cuerpos y escala de la administración general de euskadi que contemple entre otras

y esa mejor cobertura va a redundar sin duda en beneficio de la política y de la acción ambiental del gobierno vasco con un máximo de garantías necesarias para los administrados en esta materia alguien mencionaba aclima el clúster ambiental de euskadi

cerraba el artículo de la siguiente forma decía después de explicarnos toda la labor que se realiza y los problemas que hay en el departamento decía que la política medioambiental en el país vasco ha alcanzado una madurez digna de cualquier región europea por ello hoy el parlamento yo creo que en base también a esa declaración del clúster que no solamente son empresas privadas porque en el clúster participan empresas privadas las administraciones públicas y las universidades

a que adopte estas medidas para poder seguir prestando un servicio que todos queremos que sea eficaz eficiente y de calidad en materia medioambiental muchas gracias

proposamena aurkeztu zuen en nuestro grupo entendemos que la postura

soluciones reales y factibles a la situación laboral de este colectivo es la que recogemos en nuestra enmienda nuestra enmienda presentada junto con el grupo socialista

gracias al acuerdo alcanzado con el grupo proponente se recoge con algunas matizaciones en la enmienda transaccional el acuerdo ha sido posible porque tanto el grupo proponente como el grupo socialista y nosotros mismos hemos tenido verdadera voluntad de dar una solución a este colectivo concreto que en realidad se podía

a otros colectivos de la administración y teniendo en cuenta esta solución lo que se propone es siempre teniendo en cuenta sin perder de vista cuál es el marco normativo

de llegar a un punto de encuentro nos alegramos también que posteriormente

la postura de nuestro grupo consiste principalmente en dar estabilidad al personal técnico de medio ambiente del gobierno vasco también dar estabilidad igualmente apostamos por dar estabilidad al resto de la plantilla de las administraciones públicas vascas pero ahora como ahora mismo estamos hablando de esos técnicos pues nos referiremos a estos técnicos estos técnicos la verdad es que tienen una materia específica de trabajo pero su situación laboral es de lo que hoy estamos hablando pues su situación laboral no dista en exceso o no dista

de personal interino y temporal de las administraciones públicas del resto de departamentos de la administración general o de otros organismos públicos de euskadi nuestro grupo al igual que el gobierno apuesta por mantener en la medida de lo posible dentro de la organización ese conocimiento y buen hacer que se ha conseguido a lo largo de los años

la ciudadanía sin embargo tenemos que tener presente y esto es al final el marco

por la normativa vigente que ni siquiera es toda autonómica que alguna

como consecuencia de acuerdos sindicales a los que se han llegado tras su correspondiente negociación colectiva y ese es el marco que tenemos y no lo podemos desconocer ni obviamente

el marco el marco normativo concreto es el del acceso a la función pública es la normativa general de acceso a la función pública y principalmente

y se repetía en aquella comisión que tuvimos pues igualdad mérito y capacidad

en toda actuación de gobierno en nuestro grupo entendemos que la solución a esta situación de estos técnicos pasa por los siguientes puntos primero y que más o menos

el primer punto desarrollo del plan de empleo de la administración general el plan de empleo aprobado por consejo de gobierno el quince de diciembre de dos mil quince que tiene un año y medio que se aprobó hace año y medio y que está plenamente vigente este plan como ya se ha dicho junto con el plan de igualdad de mujeres y hombres

tiene un diagnóstico claro y rotundo de la situación del empleo público vasco las plantillas están primero las plantillas están

se ha dicho que la tasa de interinidad para este departamento era un setenta por ciento y eso no es así si somos rigurosos es un cincuenta y cinco por ciento porque hay que tener en cuenta

las interinidades contra vacante no el interino el que está ocupando un puesto de un fijo que está en otro sitio con eso hay que ser riguroso y sería

estamos de acuerdo que la tasa de interinidad es alta y que eso es un problema generalizado de la administración y el tercer

dentro de las administraciones públicas vascas para resolver estas cuestiones estos dos planes contemplan una exhaustiva batería de actuaciones

principalmente por aprobar durante la presente legislatura la nueva ley de empleo público vasco que cuyos ingredientes fundamentales serían los procesos de consolidación de empleo y

las nuevas escalas que se estimen oportunas y en concreto una escala para este colectivo

se preveía en el proyecto de ley de empleo público vasco en esta legislatura se entiende que es más adecuado incluirlo mediante modificación de la ley de ordenación de cuerpos y escalas

teniendo una ley específica no para el colectivo pero sí en la materia se entiende que es lo más adecuado por la entidad que tiene sin embargo tal como ha nombrado el representante del grupo popular no se entiende

aprobar una ley específicamente para un colectivo esta ley la modificación preverá la creación de diferentes escalas crear aprobar una ley solo para una escala la consideramos totalmente en este caso desproporcionado el gobierno vasco

presentar ese proyecto de esa modificación con lo cual es positivo

es un plazo máximo el camino ya se ha iniciado mediante es la orden correspondiente de julio de este año

es una limitación a su favor con lo cual entendemos que la medida es bastante

y nada suave como hacía entender el representante del partido popular además

se incluirán todas las titulaciones todas las titulaciones que la normativa europea estatal autonómica vigente

la normativa y por conjuntos de conocimientos tengan que entrar y por eso no se entiende que ha habido una discriminación si por haber sido veintisiete titulaciones que haya habido una discriminación hasta ahora no es verdad que

alguna titulación de la que se considera minoritaria minoritaria en términos de función pública y de ope pues es verdad que no han tenido

sí han podido presentarse a ope en cualquier caso se creará la escala con el conjunto de titulaciones que la normativa determine

en la presente legislatura la ley de empleo público vasco para poder incorporar esos procesos de consolidación de empleo

en las administraciones públicas en el proyecto de ley de empleo público de la legislatura pasada en las disposiciones transitorias diecinueve y veinte ya se preveían estos procesos de selección que en cualquier caso

dichos procesos de consolidación valoraban la experiencia específica además de la general siendo la específica la otorgada por la administración competente además de marcar un turno específico

para que ciertos colectivos o grupos en los que haya un alto grado de interinidad pudieran

turno diferenciado parece que el gobierno en el proyecto de ley de empleo público puede enmarcar puede mantener

esta ley la ley de empleo público vasco que esperemos que esta legislatura sí se apruebe la legislatura pasada no pudo ser aprobada no pudo ser aprobada desde luego no imputable al gobierno

a este grupo parlamentario esa ley sin esas dilaciones podía haber estado aprobada para la primavera pasada y tendríamos ya el camino abierto para poder incorporar o para que ya estarían incorporados esos procesos de consolidación de empleo esperemos que en esta legislatura

esa mesa sectorial para hablar de este tema hasta ese punto hasta el día veintiséis de septiembre había habido siete reuniones durante junio y julio que ha habido hasta cinco documentos diferentes

como ha dicho la representante del grupo socialista si se mantienen posturas

estará el punto de encuentro en cualquier caso horregatik guztiagatik uste dugu lortutako akordioan

itxaropen faltsurik sortu gabe en cualquier caso mientras este parlamento no apruebe las leyes necesarias para incorporar los procesos de consolidación de empleo

a los derechos del personal fijo de la administración en concreto al derecho a la carrera profesional en este momento los concursos de traslados y las ope son los instrumentos principales con que contamos para reducir

y rejuvenecidas que puedan seguir dando servicios públicos de calidad a la ciudadanía agradecemos

viceconsejería de función pública para poder llegar a este acuerdo además agradecemos la actitud especialmente la del señor becerra actitud responsable y práctica

para poder llegar a este acuerdo también al resto de grupos por haberse sumado eta besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko larrauri andrea erantzunen txandan

ya que él ha abierto la espita de pedirle al lehendakari cosas sobre la ley de presupuestos

que pudiera utilizar y yo no la veo mal al contrario que la señora larrauri que utilizase la ley de presupuestos para crear

algo descabellado aprovecharía para pedirle también que en la ley de presupuestos se pudieran crear al menos algunas de las plazas que esta mañana también se han mencionado en concreto las de la ley de protección del suelo que se contemplaban trece y solo hay cinco se pudieran crear las ocho restantes tampoco creo que fuera descabellado en cualquier caso

que esperamos que el gobierno respete ha dicho la señora larrauri que en cualquier caso en todos estos procesos hay que respetar los principios de igualdad mérito y capacidad y yo ya dije en la comisión correspondiente que el problema que ha tenido alguna de este personal

es que nunca han tenido ni siquiera la oportunidad de participar en un proceso de selección donde se garantizase

cuerpos minoritarios para los que en principio la administración nunca ha previsto esos procesos terminaría completando la mención que ha hecho la representante del partido socialista ha dicho que en el

de cualquier país o región europea y a renglón seguido dice es el momento de dotarle de una estructura funcionarial de la misma relevancia

peticiones de los diferentes grupos en los que marcan sus prioridades y en los que nos hablan de los recursos y bueno les hemos tenido que explicar

no tenemos o no es posible trabajar con el saco sin fondo le decía el portavoz

yo quisiera aprovechar la oportunidad que me da este turno de réplica para pedirle a los grupos

todos vamos a ser responsables de aquí a dentro de nada mes y medio dos meses máximo de poder contar con una herramienta que nos permita poner en marcha iniciativas como la que hoy se va aprobar detrás de esta votación o la que se ha aprobado esta mañana todos tenemos peticiones

que no somos capaces de levantar entre todos tendremos un problema me estoy refiriendo por si alguien no me entiende al presupuesto para el ejercicio dos mil dieciocho

tenemos una que hay que dotar de una estructura de la misma relevancia en este momento tenía la madurez de la política ambiental desarrollada por el gobierno vasco yo creo que ese es el objetivo que se marcan las dos iniciativas que sobre este tema se están aprobando en el pleno de parlamento de hoy

con respecto a suelos contaminados y unas muy concretas que es el tema de no perder el conocimiento la experiencia que se puedan prestar unos servicios de calidad en tema medio ambiental y que además se haga frente al estudio a la valoración de las necesidades de personal técnico en esta área que ya ha sido trasladado por la viceconsejería y que no desconoce

en la comparecencia por último actuar con responsabilidad nos piden o piden las partes en una mesa de negociación son dos hay que tener altura de miras por ambas partes este colectivo en este momento no está excluido del concurso de traslados porque no se hizo o no concitó

algún otro grupo de trabajadores de la administración y se ven en esta situación igual es el momento que en esos procesos de reubicación o de priorización entre el cero y el cien se tenga la altura de mira suficiente para dar protección al mayor número

algunas posiciones desde luego nosotros animamos a que esa reflexión sea por ambas partes y que se actúe con responsabilidad
en la reunión que se va a mantener eskerrik asko

se ha hecho una referencia a las privatizaciones que es el fantasma que ronda siempre cuando hablamos de la administración pública

no hay privatización de la administración y las externalizaciones si las hay son puntuales pero desde luego para nada tienen que ver con el tema

en relación a la recolocación tras el proceso de concurso de traslados

que pudiera quedar desplazado que además ya sabemos que quince de los puestos de los técnicos del medio ambiente no han sido solicitados por nadie pues

ha habido diferentes se ha trabajado en diferentes borradores hasta el mismo martes

según sus palabras el texto cumplía el objetivo que nos habíamos marcado que nos habíamos propuesto cuando nos pusimos a negociarlo que es el de minimizar al máximo si no anular por completo los efectos negativos sobre el personal desplazado es la opinión de un sindicato que mi grupo la comparte sin embargo a última hora pues parece

y que debido a otras posturas maximalistas de cero y el cero no se puede garantizar pues no ha podido salir adelante en cualquier caso esas personas volverían en el peor de los casos a unas bolsas de trabajo en el que con el sistema ordinario hay una rebaremación que seguro que esas personas que llevan tantos años en el caso de salir a bolsas de trabajo que lo dudo

que no saldrían tan mal paradas en cualquier caso siempre el gobierno siempre está buscando soluciones para poder mejorar situaciones y para poder

la iniciativa que presento en nombre del grupo popular pretende ser una defensa y apoyo del sector turístico en euskadi ante la campaña de ataques que en plena temporada turística se han producido en las calles de nuestras capitales principalmente en las capitales

leer noticias sobre los ataques en bilbao contra la agencia vasca de turismo basquetour al día siguiente en san sebastián capital vasca con mayor potencial turístico en nuestra comunidad en cuyas calles de la parte vieja se produjeron

con carteles y pintadas con el mensaje de fuera turistas e incluso invitando

a visitantes foráneos todo un

toda una campaña radical orquestada contra el modelo de turismo en euskadi con manifestaciones en las tres capitales en sus fiestas

y hemos cambiado este año se ha elegido el turismo manifestaciones en las que se acusaba a partidos políticos de asesinar al pueblo a la vez que ensalzaban a los presos de eta todo ello con el objetivo de boicotear la temporada turística en euskadi imitando

lo fácil lo torpe con ataques violentos a turistas hoteles trenes y autobuses turísticos etcétera

esto tampoco es nuevo entre sus filas la de los

ya desde finales de los sesenta la llegada del turismo a españa

por lo que el turismo podía aportar al desarrollo económico de españa y esto era malo muy malo para asentar sus objetivos políticos

por eso recomendaban en su catecismo aplicar ciertas medidas de terrorismo contra turistas de otros países entonces aún

lo que entonces llamaban aplicar medidas de terrorismo ahora se llaman señorías hechos desafortunados cómo han cambiado el lenguaje en definitiva entonces y ahora frenar el desarrollo económico de euskadi

es un mejor escenario una euskadi con poco desarrollo económico

están para someter a los vascos mediante la mentira y la extorsión a sus propios intereses políticos pretenden hacernos creer que de este ataque organizado a la economía vasca y a miles de empleo ustedes

han sido los mocetes estos que andaban por la calle ustedes de ejercicios espirituales seguramente como es lo habitual porque no sean falsos

ustedes se nutren del ruido y de la agitación porque desconocen otra forma de hacer política y para que no se vea su incapacidad tienen la necesidad de crear desestabilización nos han presentado

masificado donde se ejerce un negocio salvaje

les dio datos de ranking de masificación por comunidades autónomas euskadi ocupa el puesto catorce de las diecisiete autonomías por puntos turísticos de los ciento cuatro que se valoran donostia el sesenta y dos vitoria el noventa y tres hablamos de índice de intensidad turística un tres coma cinco por ciento

ocupamos el puesto dieciséis de las diecisiete comunidades autónomas

bilbao doscientos sesenta y cuatro creo que cogí bien los datos

por mil habitantes no tenemos turismo masivo y estamos muy lejos

de cifras como por ejemplo nos decía el señor consejero peñíscola con nueve mil

por qué se distorsionan los datos por qué se cuentan mentiras

y los arropan y los agitan y sacan la pancarta

avanzando ayer la comparecencia del señor consejero y ante la rotundidad de los datos se fue cercando el problema y llegamos a san sebastián

y más concretamente llegamos a la parte vieja de san sebastián parece que

mes y medio resulta que ya lo localizamos ayer y lo situamos

de san sebastián pero hay que decir que

por ejemplo en la legislatura anterior del ayuntamiento de san sebastián hubo un alcalde

por ejemplo ese el modelo del alcalde de aquel momento

organización política pertenecía este señor y por qué reniegan tienen algún problema con aquellos hechos tienen un debate todavía sin desarrollar interno vale pues si lo tienen lo hagan pero no nos

con ese debate hablaba ayer el representante portavoz de eh bildu de un debate cosmopolita cuando lo hagan ustedes y se pongan de acuerdo entraremos todos a un debate tantísimos años suspirando por elevar

a destruir un sector que crece de manera exponencial un treinta y ocho por ciento

en san sebastián representa el trece por ciento genera

millónes de euros al año y esto es gracias a la constancia

en su mayoría que han pasado unos años muy duros ante la presencia de eta que cuando empezaban a salir de ese

llegó la crisis y que cuando estamos saliendo de la crisis llegan ustedes

del turismo en el país vasco no entendemos cómo son capaces

mala imagen de euskadi a atacar a un sector importante de la economía vasca

empleos y puestos de trabajo que pueden estar puestos en peligro señorías esta ha sido la realidad de euskadi en el país vasco

durante este verano durante mes y medio hasta que como decía ayer el señor consejero llegó el diecisiete de agosto y unos

nosotros presentamos una iniciativa porque creemos que no se merece el turismo vasco que esté pasando esto esto no se puede tolerar y aquí quien

una reflexión y no ha condenado estos ataques al sector turístico y eso nos parece muy fuerte nosotros presentamos esta iniciativa el dieciocho de agosto los grupos han presentado enmiendas a esta iniciativa

socialista y grupo nacionalistas vascos en el que además de hacer una condena a estos actos de respaldar al sector turístico

cuál debe ser parte de los ejes del turismo en el país vasco

decimos el parlamento vasco manifiesta su apoyo a los trabajadores empresarios y autónomos del sector turístico vasco

que contribuye a la generación de riqueza y empleo

inclusivas y tolerantes el parlamento vasco condena los hechos violentos y las coacciones que han tenido lugar este verano

turistas y edificios públicos en el contexto de una campaña que lejos de promover ningún debate solo servía para proyectar una mala imagen de euskadi

en que el turismo evoluciona a mantener su apuesta por la sostenibilidad turística en un entorno también el parlamento vasco insta al gobierno a que prosiga su labor de un turismo sostenible equilibrado ordenado de calidad respetuoso con el medio ambiente con nuestro modo de vida y nuestra cultura

entre partidos e instituciones y contando con todos los agentes del sector creemos que es una iniciativa importante porque se puede

inmensa mayoría de esta cámara que tenga una mínima sensibilidad por un sector turístico tan importante como es el sector del turismo en euskadi

turísticos en euskadi la generamos los propios vascos la otra mitad

más de cincuenta y siete millónes de euros los de fuera esos que son de fuera y que no queremos que vengan pues nos dejan al mes cincuenta y siete millónes de euros creo que es algo no desdeñable y como decía antes los más de cien mil empleos que generan y otras dinámicas

a esos que despachábamos y que nos permitimos el lujo de maltratarlos y yo me pregunto ustedes cuándo van fuera qué hacen

el traje típico del lugar para integrarse o qué pasa de verdad que nos parece que son técnicas y modos muy antiguos muy rancios que creo que lo que deberían de hacer es que todos contribuyamos a que en euskadi tengamos

turístico que sea el mejor respetuoso sostenible pero que nos genere economía que es lo que nos falta y el sector turístico que ha pasado

en este país pues pueda por fin coger vuelo y ser un motor de la económica

arratsalde on lehendakari jauna y buenas tardes a todas las parlamentarias nos encontramos con este último punto del pleno que ha presentado el grupo popular relativo

que discutimos hoy trata de confundir y servirse de los actos que menciona que siempre hemos rechazado con claridad

este pasado verano el debate sobre el modelo turístico que es también el debate sobre el modelo de ciudad y sobre la planificación urbanística es el debate que ayer intentamos tener en la comparecencia del señor retortillo

que este debate se haga en profundidad reducir este debate a fórmulas por suerte superadas y pedirnos que abracemos el modelo turístico actual

en el que las condiciones laborales de personas trabajadoras dejan bastante que desear nos parece que es venir aquí a hacer el trabajo no se trata hoy no se trata de sacar hoy una pnl con un titular como el que quieren quienes no están dispuestos

al fondo del debate sino de tener la oportunidad de traer a esta cámara un debate que lleva años produciéndose en la sociedad civil igual

pero nosotras hemos participado del mismo como muchas vecinas de donostia bilbo gasteiz y otros pueblos y ciudades de euskadi hay que salir más a las calles y a las plazas y escuchar a la gente debates y resistencias

al precio que sea es evidente como la defensa de los proyectos sociales y culturales autogestionados

a la que hemos asistido con la excusa del manoseado progreso y la fiebre constructora de algunos gobiernos municipales más preocupados por construir un zoo arquitectónico para turistas que por la conservación

se puede decir más claro el aumento del turismo que este verano ha alcanzado

de las políticas urbanísticas y de un modelo de ciudad que ha sido impulsado desde el gobierno vasco y los gobiernos municipales de las capitales vascas desde hace algunos años

llevó el nombre de euskal hiria la ciudad vasca global creo que le llamaban sobre los actos violentos ya lo dijimos y lo volvemos a repetir

que nosotras defendemos las acciones pacificas de la sociedad civil en forma de protesta no vaya a ser que empecemos a prohibir también esto protestar es un derecho y a pesar de que algunos se empeñen en aplicar leyes mordaza y medidas de represión lo vuelvo a repetir

por el amarillísimo en esta cuestión sirve para eludir una realidad

dándose un debate de carácter global ante la aparición de nuevos fenómenos vinculados a la actividad turística simplismo y simplificaciones el turismo

sobre estos dos aspectos hace años que se produce un debate social con ejemplos muy claros de oposición en la sociedad civil

tranvía sur no debates sobre la dot etcétera quizá

sean referenciales al menos para ustedes pero déjenme citar

del turismo de hace unas semanas cito textualmente el modelo turístico se debe replantear por completo el crecimiento sostenible y ordenado

y desafortunadamente en el mundo desarrollado cada vez hay más ejemplos como los de barcelona y venecia incluso a escala bilbao

hablamos de la necesidad de hacer un debate serio y profundo sobre el modelo turístico y sus consecuencias o prefieren optar por el amarillísimo comunicativo y el lobismo legislativo por otra parte ya que en su pnl nos invitan a apoyar al sector turístico y a sus trabajadoras

sobre la realidad de este sector que por fortuna no representa la totalidad del mismo pero sí una parte

como hemos sabido esta misma semana y como ya apuntó hacienda al inicio del verano una cifra que asciende a unos tres coma dos millónes de euros las cifras de economía sumergida en el sector turístico que como sabemos es una de las más altas en relación con otros sectores económicos hay un informe

resulta llamativo que prácticamente una de cada cinco inspecciones realizadas en empresas vascas en los últimos cuatro años han encontrado personas

en la seguridad social o lo hacían más horas de lo fijado en el contrato

en la hostelería trabajadores y trabajadoras a prueba a tiempo parcial y cobrando en b el resto de la jornada

sin declarar ya lo hemos dicho muchas veces queremos un turismo de calidad pero un turismo de calidad debe conllevar un empleo de calidad mejorar las condiciones de trabajo en el sector debería ser una prioridad reducir por tanto

es un insulto a la inteligencia y una falta de respeto a la ciudadanía es obvio

sirve a otros intereses que desde luego no son los nuestros nosotras planteamos que se hable de los impactos y consecuencias del turismo de todos y cada uno de ellos

sino a que se plantee este debate con la seriedad que exige el asunto

o de localidades costeras han empezado a sufrir las consecuencias de esta puesta

sino que los propios turistas son una víctima de un mecanismo económico en que participan como actores y figurantes el nuevo modelo de turismo pasa por promover

que es aquel que propicia las relaciones interculturales directas e igualatorias entre los turistas y las poblaciones visitadas es momento de reivindicar un tiempo en que las personas viajeras

con las clases populares de la ciudad ante su propuesta nosotras presentamos una enmienda transaccional junto con eh bildu donde apelamos a que el gobierno vasco

económico social y cultural de los fenómenos turísticos en algunos puntos que se impulse un foro de debate plural que cuente con todos los agentes del sector y que se tomen en consideración los estudios y análisis existentes sobre las consecuencias negativas y las reivindicaciones de la sociedad civil que se cumpla la ley de turismo y que se tomen medidas

de las trabajadoras del sector nosotras estamos dispuestas a trabajar en este sentido debatir sobre el turismo desde la coordinación interinstitucional repensar entre todas el modelo que tenemos y entender cómo afecta a la vida de todas las personas que convivimos en euskadi

preparado para rebatir o tratar de rebatir los argumentos de la señora lópez de ocariz pero me ha ahorrado el trabajo porque en vez de ella se ha presentado su auto caricatura y con una colección de clichés

de inter economía de trece te uve pues bueno nos ha hecho pasar aquí un buen rato

está en otra dimensión por tanto me ahorro en tratar de rebatir porque realmente con fundamento y con sentido ha dicho bastante poco pero sí me voy a dirigir al señor y decirle oiga con esta intervención

usted va detrás el partido nacionalista vasco va detrás

así se va a construir turismo así se van a defender los intereses de este país de este sector económico usted sabe cómo se portó el partido popular

con el sector del turismo y donde hay un ejercicio de demagogia infumable y sin embargo ustedes hoy firman a rebufo del partido popular que nos ha deleitado con este discurso una moción en la cual dicen compartir líneas de cómo desarrollar el turismo creo que ese es un camino equivocado uda honetan egon dira

aste hauetan gezur pilo bat han dicho que hemos dicho un montón de cosas que no hemos dicho se nos ha tratado de tapar la boca de ocultar lo que realmente venimos diciendo durante el turismo y poner en nuestra boca

han dicho y con un interés muy claro porque como decía el señor alcalde las pintadas se tapaban y no se decía nada

de hacer carroñerismo político y de atacar a eh bildu con este tema y otra demostración

la vivimos ayer durante la peculiar comparecencia del consejero de turismo en la cual traía preparadas en su intervención en su power point

a eh bildu con imágenes de este parlamentario con citas de este parlamentario y con elementos diversos destinados a comparecer para atacar a eh bildu esto es lo que ustedes están haciendo me parece bastante rastrero entre otras cosas

y por lo que hace sino por lo que ustedes se inventan que dice y que hace y además se ha iniciado una campaña que como bien

de elkarrekin podemos trata de llevar a la pira a cualquier persona que ose poner en cuestión el modelo turístico imperante

de que lo que se está haciendo se está haciendo bien y de que cualquier crítica es retrógrada y es turismofoba y también se trata de aplastar

con críticas con las que se puede o no estar de acuerdo pero que son perfectamente legítimas no vamos a permitir que se achique el espacio

cuestiones que pueden gustar más o menos pero que son perfectamente legítimas qué hechos violentos estamos hablando

ya sabemos que la macarena puede considerarse un arma de destrucción masiva pero eso es un hecho violento

pero no es un hecho violento cuando green peace se descuelga de una central nuclear o se para un convoy de residuos radiactivos y se generan muchos miles de euros de pérdidas

amenazas ataques o insultos que eh bildu no defiende en ninguna de las formas y expresamente décimos

desde el primer momento nosotros décimos tourist welcome to the basque country nosotros no décimos tourist go home nos parece absurdo pero oiga

en agosto hemos sacado un artículo expresamente diciendo esto mismo todos somos turistas en este país casi todos yo creo que todos los que se lo pueden permitir y por tanto insultar a los turistas

absurdo entre otras cosas además de rechazable absurdo ese tipo de pintadas pero eso no nos tiene que llevar

a mezclar las cosas porque parece que algunos cumplen un poco el papel del necio en la parábola del dedo y la luna y cuando efectivamente se hace unas críticas al modelo turístico se queda mirando al dedo y se queda mirando a las formas ha mencionado y no voy a leer la cita entera pero ayer en la comparecencia del consejero tuve oportunidad de leerla

mundial del turismo el modelo turístico se debe replantear por completo esto qué es violencia esto es

generando nuevos problemas en torno al turismo a los que hay que dar nuevas respuestas porque el paradigma del crecimiento ilimitado es en estos momentos un paradigma

ni de vanagloriarse porque el turismo esté creciendo de forma exponencial sino de gestionar de forma correcta ese crecimiento y moderarlo y encauzarlo de tal forma que no genere más problemas sabe lo que decían los vecinos de la parte vieja

pero cuando los vecinos de una sociedad además que ustedes conocen perfectamente

está harta de la situación que está padeciendo en el barrio dicen la parte vieja se descompone el espacio público se privatiza se transforma el barrio en un parque temático

y se convierten en mercancía todo ello porque la primacía económica de un sector la industria del turismo y del ocio arrasa con todo este es el llamamiento que a ustedes les hacen este es el emplazamiento y ustedes lo niegan niegan que haya pisos de masificación

por supuesto que no hay masificación generalizada pero es que es una obviedad pero sí hay puntos en los que hay masificación y desde la primera comparecencia el señor consejero tienen ustedes un germen de problema actúen ante el germen de problema antes de tener el problemón y en vez de actuar lo que ustedes están haciendo negar la mayor

de actuar mire le voy a leer otra frase las ciudades están muriendo por el turismo nadie vivirá más en los centros históricos muchas ciudades históricas más pequeñas en europa están siendo destruidas por los visitantes no gastaremos ni un euro más en la comercialización de ámsterdam esto no ha dicho alguien de ernai

las ciudades están muriendo por el turismo el responsable de la promoción turística de ámsterdam es el que ha dicho esto y por tanto ustedes lo que hacen es mirar a otro lado miren

esto es un debate global este es the guardian este es el economista en prensa

se está hablando sobre la necesidad de reenfocar el modelo turístico y por tanto pedir

sino que es necesario y la histeria y la reacción inquisitorial con la que se ha actuado este verano ante unas protestas mezclándolo todo mezclando protestas legítimas

puesto encima de la mesa eh bildu lo que demuestra es su cerrazón y así no se defiende el turismo

a la que había en los momentos previos al estallido de la burbuja inmobiliaria

hombre claro que sí pero hay que saber encauzar el crecimiento para que luego no nos estalle entre las manos y el derecho a hacer turismo no se convierta en la imposibilidad por ejemplo

o de acceder a un trabajo digno la palabra precarización en el sector

nadie habla de precariedad cuando nosotros introdujimos en la ley de turismo la necesidad de que fuera un eje trasversal en las políticas turísticas y nosotros seguimos respaldando la ley de turismo pero como dijimos en junio el problema es que no se está cumpliendo y nosotros exigimos

nosotros seguimos comprometidos con un modelo sostenible de turismo

y de nuestros actos en sede institucional o en otros ámbitos a través de euskal herria bildu

falsamente cosas que no hacemos ni décimos y nosotros a diferencia de otros que vienen aquí a montar el show

serpiente del verano porque ya no estamos en verano estamos a veintinueve de septiembre o

la polémica esta finiquitada ahora la sociedad está hablando de temas importantes relacionadas con el turismo como es la tasa turística como es los pisos turísticos y ya esto está finiquitado los propios miembros de las asociaciones de turismo que se reunieron con el consejero le dijeron

le dijeron no esto las aguas volverán a su cauce y no vamos a darle más relevancia a este tema sin embargo otros por puro interés político dicen se quejan de que ese proyecto nos da mala imagen y luego proyectan acciones muy minoritarias y rechazadas por todos los partidos políticos como si fuera

y por lo tanto tengan que ser apercibidos para el cierre y para terminar con esa actividad que no cumplen los requisitos sean también informados
sus propietario y propietarias de la posibilidad de derivar al mercado amaitzen joan del alquiler residencial esos pisos para conseguir que efectivamente

ponerse al servicio del alquiler y pueda aumentar la oferta y reducirse los precios

presidenta buenas tardes los socialista vascos hemos

con la sola intención a nuestro modo de ver de atacar a un sector económico generador de empleo y riqueza en euskadi

de empleo y riqueza en euskadi que supone el seis por ciento de nuestro producto interior bruto y el diez coma siete por ciento de los afiliados a la seguridad social

en el segundo semestre del año un ámbito que genera además cuatro mil cien millónes de euros anuales y que crea casi

ayer compareció el consejero de turismo comercio y consumo en la comisión para responder con la visión y las políticas de su departamento

que este verano algunos se han empeñado en arrojar sobre la actividad turística en euskadi a partir de una lamentable campaña de la que solo son responsables quienes la sustentaron

y quienes la aprovecharon para promover sus postulados políticos lo que realmente estaba atacando

era la economía vasca y los miles de empleos de los trabajadores y trabajadoras vascas compartimos con el gobierno la visión de que tenemos que dejar de ver el crecimiento del turismo en base a records de visitantes y centrarnos más en

a la economía vasca y en cómo incrementar y mejorar su aportación económica y de empleo porque hay margen de crecimiento y pese al aumento en la llegada de visitantes

en euskadi de hecho tal y como revela el último estudio del gobierno vasco en colaboración con la universidad de deusto no existe en la sociedad vasca una percepción de saturación turística como ocurre en otros lugares de españa y ayer pudimos ver en esa comisión

y de plazas hoteleras del país vasco y de ciudades vascas

que no dejaban ninguna duda sobre la no existencia de masificación turística en euskadi y los socialistas creemos que euskadi

sostenible de un turismo equilibrado territorialmente y comprometido con la protección de su patrimonio natural y cultural y de hecho eso es algo que los socialistas venimos trabajando desde todas las instituciones en las que tenemos presencia

al fundamentarse en la sostenibilidad el equilibrio por el territorio y en la desestacionalización miren hasta hace poco

lo decía también en este salón de plenos que a día de hoy el turismo no es percibido como una amenaza por la mayoría de la sociedad ni se tiene la conciencia de que exista un exceso de turismo

y esto es así básicamente porque no existe y leo literal y yo entonces compartía con usted señor casanova este planteamiento llegamos incluso a pactar con ustedes esa propuesta aprobada por unanimidad de los presentes sobre un tema que podía preocupar a la ciudadanía vasca

pero las razones de lo ocurrido en verano son ajenas al turismo y usted lo sabe no estamos ante un debate necesario porque ya fue abierto aquel debate analizado de resolución me refiero a las viviendas de uso turístico los socialistas estamos abiertos a dialogar siempre sobre cualquier asunto o problema que la ciudadanía

razonable y sereno pero lo que en ningún caso admitimos son actos vandálicos y actos de imposición que lo único que han pretendido

sino cerrar puertas dar portazos y en la ley de turismo de euskadi apoyada también por bildu los principios en los que se basan las políticas turísticas veintiuno por cierto veintiuno principios son lo que realmente configura el modelo turístico por el que hemos apostado y por el que usted también a través de esa ley de turismo y cuando unos irresponsables dañan un destino turístico lo que consiguen además de tirar a la basura unos recursos económicos

conseguir es que además los turistas se vayan a otros destinos no quieran volver aquí o no quieran repetir la experiencia y la apuesta

del gobierno vasco es la de promocionar un turismo sostenible incrementar la estancia de los visitantes

que además fluyan hacía el conjunto de la población y no se concentren solo en algunos puntos del territorio y que se genere en definitiva estable y de calidad en el sector y la ciudadanía vasca es mucho más consumidora de turismo que receptora mucho más y a nadie nos gustaría

con pancartas con pintadas o con carteles que nos manden a casa no nos gustaría y no nos gusta que nos coaccionen y no nos gusta que nos amenacen

menos por el hecho exclusivamente de ser turistas y lo que no queramos para nosotros

el turismo es un motor para el desarrollo industrial y económico

y con la convivencia porque promueve el entendimiento multicultural y hemos de tener en cuenta que desde los años setenta hasta hoy la industria turística mundial es la que más

ha generado en el mundo y por eso hemos presentado esta enmienda de transacción porque entendíamos que era necesario manifestar nuestro apoyo a las personas que configuran

personas empresas trabajadores que son parte activa en la creación de riqueza de este país

suponga ese seis por ciento del producto interior bruto en euskadi y que no han echado la toalla cuando ha venido un periodo malo como la crisis que hemos venido padeciendo por eso condenamos los hechos violentos las actuaciones y las amenazas

y animamos y apoyamos al gobierno señor consejero a proseguir

que para un turismo sostenible equilibrado ordenado y de calidad cuenta además que además cuenta con amplios consensos entre partidos e instituciones y con todos los agentes del sector y respeto a la iniciativa que ha planteado elkarrekin podemos

la tiene el desarrollo urbanístico de las ciudades y a mí me gustaría poner en solfa ese planteamiento porque creo que no es verdad porque creo que en la ciudades por ejemplo en san sebastián que es la que mejor conoce y perdónenme

hacia ese campo es una ciudad que ha tenido un desarrollo muy sostenible sus pegas sus problemas pero muy sostenible

toda la vida toda la vida la parte vieja de san sebastián ha sido el primer barrio de todo donosti que tuvo un plan de rehabilitación integral para que la ciudadanía que allí viviese lo hiciese en perfectas condiciones todo es mejorable

hay situaciones que requieren de una mayor atención pero no es la parte vieja en este momento señor casanova la que realmente tiene el problemón no es verdad y soy testigo de cómo se ha desarrollado el barrio de la parte vieja testigo de primera mano y le puedo asegurar que reivindicaciones ha habido siempre

otro orden de cosas creo que aquí en algún caso decía

la boca a bildu bueno yo le diría que las cosas no se pueden tomar

al menos en mi grupo tapar la boca a bildu pero mire lo que ha ocurrido no se puede dejar pasar de soslayo como si no hubiese ocurrido nada porque ha sido grave ha sido muy grave y usted decía que hablaba de hechos violentos bueno le comento el señor matute que pertenece a euskal herria bildu en radio euskadi

intentando un poco hacer la gracieta pues bueno su propio compañero de partido o de coalición le decía que dijo que lo del ataque había sido en el tren txu txu perdón había sido un ataque él lo dijo un

y el señor otegi una semana después de bromear con el primer día de los incidentes con aquello de lo de la macarena

nos vamos marcando un camino que yo creo que es peligroso porque decir que bueno como ha pasado ya no pasa nada no a los hechos

nunca más y yo tengo la impresión de que con la actitud que se ha adoptado hoy aquí no vamos a conseguirlo es decir mañana el turismo puede ser otra vez

tan solo porque vencerán a intenciones espurias de algunos grupos o partidos políticos y respecto a la enmienda que han presentado que al final es una suma entiendo de lo que planteaba bildu y lo que planteaba la

de elkarrekin podemos yo les digo no la vamos a asumir primero porque entiendo que se está intentando amparar en la falta de libertad de expresión unos ataques unas amenazas y unas coacciones que no tienen amparo

de expresión en segundo lugar porque no compartimos ni el segundo punto ni el tercer punto luego igual en la réplica les doy un poquito más porque ya veo que acabo el tiempo pero

que en lo que se refiere al tema de los convenios sectoriales del cumplimiento de la ley en la cuestión de empleo la consejera de trabajo y justicia precisamente ha iniciado

de situaciones que puedan ser conflictivas en cuanto a materia de contratación y porque entiendo que no hace falta instar al consejero a que cumpla la ley de turismo porque desde el minuto cero de su mandato y de que adquiriese la responsabilidad como consejero de turismo ha tenido la ley puesta

y porque quizás fuimos estos parlamentarios y parlamentarias que estábamos julio del año dos mil dieciséis del año pasado los que fuimos incapaces de plantear en aquella ley de turismo el desarrollo que hoy se ve obligado el consejero a realizar más de doce desarrollos reglamentarios en una ley si hubiéramos podido hacer e implicar a la ley de antemano

viendo hoy aquí podrían haberse solucionado con esa ley que no fuimos capaces de tenerla

legebiltzarkideok arratsalde on guztioi señor casanova el pnv y el grupo euzko abertzaleak es responsable

ha reivindicado también para sí ese derecho por lo tanto concédalo también a los demás bueno atzo izan genuen

es una ciudad con ciento cincuenta años de tradición turística ciento cincuenta años que

que puede estar bien o puede estar mal pero

el centro centro de la ciudad alberga como ocurre en otras muchas ciudades la mayoría de los acontecimientos festivos que se organizan en la ciudad y eso provoca evidentemente una serie de

y también en su caso beneficios habría que hablar de los excursionistas es decir cuando hablamos de los turistas

quien provoca si se quiere aglomeraciones son los excursionistas o sea somos nosotros incluso los de la provincia o si me apura

hasta santander bajando a burgos tutera que

a cenar a la sociedad yo tengo mi sociedad en donostia y en la parte vieja vamos a hacer compras vamos a pasear hay muchísima gente que va a donostia a pasear y es un poco

digamos ese tipo de aglomeraciones a parte de que también lo que provoca son

copados por nosotros y organizados por nosotros mismos como pueden ser efectivamente las regatas como puede ser el día de san sebastián como puede ser el día de santo tomás como puede ser el día de las fiestas vascas o el sagardo eguna de hecho le voy a decir

se ha producido una reunión pero una de tantas no la primera y no por ernai una reunión del ayuntamiento con

de los vecinos de la parte vieja y el ayuntamiento impulsa dice el titular de un periódico un plan integral para la gestión de problemas de la parte vieja y esa misma pero que no es la primera vez y esa misma asociación tiene dicho porque efectivamente son plurales y no se dejan manipular tampoco por ernai aunque lo pretenda

que el turismo no es el problema que o digamos el detonante de todos los problemas que tiene la parte vieja sino que son otros muchos por tanto las cosas un poco

y a decir verdad en cuanto a los alquileres y ayer nos mostraba usted un gráfico yo la verdad

el problema del precio de los alquileres y de los pisos en términos de compra nuevos o segunda mano es un problema que yo siempre lo he conocido

siempre ha existido ese problema por determinadas condicionantes entre otros

segunda idea sobre la que se ha basado toda esta campaña que en mi opinión es falsa gure herriaren hazkunde ekonomiko eredua

programatu zen hori eta planifikatu egin zen desde principios de los años noventa las instituciones vascas con el gobierno vasco a la cabeza estableció como objetivo estratégico el seguir siendo una sociedad eminentemente industrial

fuese el veinticinco por ciento industrial y que también en términos de empleo

y usted sabe el turismo qué peso tiene en estos momentos sí lo sabe es un seis por ciento

y decir que uno nosotros ponemos la alfombra roja al turismo salvaje y que pretendemos algo así como modificar nuestro modelo de crecimiento económico y parecernos no sé si a baleares que cuyo pib

gezurra gero ez dela ezer egin no se ha hecho nada pues no eso

y ayer se lo dije y hoy lo vuelvo a repetir el consejero desde que llegó a sus responsabilidades y así lo manifestó en esta cámara en enero

desde febrero lleva reuniéndose con los diferentes actores institucionales para abordar este asunto por lo tanto no es ernai ni de lejos

de cara a intentar arreglar este asunto de los pisos turísticos ilegales

inoiz uko egin y ha habido discusión ha habido reflexión ha habido intercambio de opiniones

y su artículo de prensa decía el turismo un debate necesario como si fuese ernai otra vez más

y no no este debate ha existido prueba de ello es la propia ley la propia ley que se aprobó en julio del año pasado y que previamente lógicamente

de discusiones y reflexiones su propia proposición no de ley moción consecuencia de interpelación al consejero

por tanto no es ernai ni muchísimo menos quien ha sido el detonante para que las instituciones se ocupen de este asunto que es el asunto principal que causa problemas que es el de los pisos turísticos ilegales sino que las instituciones ya estaban en ello

tenemos este mismo lunes que el consejero ha firmado un acuerdo marco

para abordar ese asunto las capitales vascas donosti ya tiene lanzado digamos su decreto que está ahora en apertura pública etcétera etcétera digamos exposición pública perdón para recibir

por lo tanto todo esto se ha sustentado en cuatro premisas que no son ciertas y usted ayer criticaba de una manera incluso personal

personal y luego se extraña de que el consejero reaccione

dan para mucho aquí y ayer y hoy usted le ha criticado que se pone de perfil y que llega tarde y mal aquí quien se ha puesto de perfil precisamente y quien ha llegado tarde y mal es eh bildu

porque eh bildu y sortu tienen responsabilidad

y sabe por qué porque ustedes no han sido capaces o no han podido convencer o explicar adecuadamente a ernai parte vieja de donosti que se estaban

de primeros protagonistas para atajar el problema de los pisos turísticos y que existen cauces institucionales y no pintadas ni ataques ni este tipo de historias porque eso no es ya se el ataque de pearl harbor pero tampoco es una rueda de prensa

pues que existen cauces institucionales para abordar todos esos asuntos y que se estaban abordando no fueron capaces ni de convencerle insisto

consecuencia de interpelación ustedes fueron responsables eskerrik asko uribe etxebarria jauna

señora garcía en veinticuatro horas ha pasado usted de señor consejero escuche

a le he entendido un debate en la intimidad pues es sorprendente no sé me ha parecido y digo bueno me ha parecido escucharle lo ha dicho

un debate en la intimidad pasamos de escuchemos a la gente a un debate en la intimidad vale bien

han pasado a imponer ustedes se van transformando que está bien hagan lo que les parecen oportuno pero

nada más y hablaba de situaciones ilegales en contrataciones

puede haber claro que sí pero hay medios y cauces para denunciar eso no creo que eso justifique

por lo tanto no pretendamos justificar lo que ha pasado con estas cuestiones porque estamos hablando como se hablaba de negocio salvaje oiga vamos a justificar las cosas el daño que estamos haciendo nos repite lo del modelo de turismo mire hay varias formas de hacer turismo tantas formas como seamos capaces de ofrecer y el cliente de aceptar y ese modelo será el que tenga éxito o no

que todo modelo o tipo de turismo que se haga tiene que cumplir unos parámetros básicos que es lo que décimos los ejes de sostenibilidad

y de control de control y reglado y respetando los derechos de los ciudadanos

que luego es experiencial pues si o no o tres días sí y cuatro no

señor casanova llevo unos cuantos años en esta cámara y aquí se hacen acuerdos

nunca había visto pedir un peaje a un partido político a un grupo por haber apoyado una ley nunca había visto como ha hecho usted hoy

innovar nunca había visto algo parecido señor casanova

eh bildu se postula como mediador para regular el turismo agosto dos mil diecisiete pero es que

no ha sido capaz de transmitir a sus compañeros que el turismo está regulado por ley que es que la votó usted y además decía la formación

oiga los hosteleros una profesión una actividad que la dejó usted

que no es calificada como actividad turística no sé igual tiene alguna explicación

se está desarrollando muchos reglamentos pero regulado está o no o

bueno hay algo que es preocupante que hemos tenido jóvenes como trofeo ataques a recursos turísticos y eso es muy fuerte y eso es una alarma porque eso es contagioso eso

y eso sí que les debería de preocupar a mí por lo menos me preocupa creo que ahí tenemos un problema importante mire el turismo ha sido un sector y es un sector básico que ha superado

que nos aporta unos recursos económicos como decía antes impresionantes

y a ustedes eso no les preocupa les parece más menos

mire nos ha costado mucho recuperar la calle a los ciudadanos vascos y a los que nos visitan por lo que no podemos permitir que unos brutos

la calle intimidando a propios y extraños creo que eso no lo podemos permitir nadie desde luego nuestro trabajo

haya un solo hecho de ese tipo lo denunciemos y le parecerá a usted que damos pábulo pero

nos quieren hacer creer que las críticas a este modelo de turismo se han producido solo este verano

yo creo recordar que al menos desde que yo estoy en esta cámara hemos puesto sobre la mesa la necesidad de replantear y reenfocar las políticas turísticas

de cito literalmente sensación de lleno de muchos ciudadanos y muchas ciudadanas

y otros más no es un debate del verano es un debate que ya viene de lejos no podemos coger unos acontecimientos y tratar

vamos a hablar de modelo turístico queremos seguir negando esta realidad

porque todo responde al modelo que es más rentable económicamente o somos capaces

aseguran de ver la realidad que viven algunas de nuestras vecinas y trabajadoras del sector turístico queremos realmente un equilibrio entre la vida de los turistas

o queremos seguir manteniendo un modelo rentable señora

usted habla de clientes y yo prefiero hablar de viajeras y de viajeros cuando quiera que antes no lo he dicho nos sentamos y hablamos esto en la intimidad

pero antes en ningún caso lo he dicho hoy mismo

en torno a la tasa turística una medida de control que bajo nuestro punto de vista ayudaría sin lugar a dudas a regular creemos que esto es parte de una política

y de seguir escondiendo el debate real el debate al que nosotras estamos dispuestas a tratar el debate del turismo porque hoy parece que hemos venido a hablar de otra cosa pero yo

quiero que sigamos hablando del turismo por favor muchas gracias eskerrik asko garcía

precisamente que los problemas no se pueden resolver si ni siquiera se reconocen y ustedes siguen insistiendo en no reconocer cosas que desde mi punto de vista son más que evidentes y uno de ellos el tema de los alquileres por supuesto que donostia es una ciudad cara que siempre ha habido un problema de la vivienda

esta parte roja es lo que ha crecido en los dos últimos años y es verdad que porque la gente no puede acceder a hipotecas por encarecimiento de crédito etcétera etcétera

ha subido de forma exponencial y claro yo le decía que hay otro gráfico que es el de los pisos turísticos en todo el estado y como comprobará

y le dije al señor consejero que somos del mismo pueblo que ya se el tiempo que hace aquí que aquí de sol poco vamos a vender y más después de este verano pero sí que hay un problema emergente

esto es el mapa de los pisos turísticos aparte de la costa hay tres ciudades que son sevilla madrid y donosti entonces si yo cojo esto y cojo esto

al mercado turístico ha hecho que se encarezca porque disminuye la oferta de pisos para alquiler y si además los vecinos de la parte vieja de donosti dicen que donde más ha subido el precio

de un crecimiento incontrolado de pisos turísticos con la subida de los precios de alquiler usted negaba otra evidencia decía la parte vieja no está masificada pro que es que la gente nos vamos a tomar potes después de las estropadas hombre pues sí pues sí hay sitios en los que pasa eso pero si es que eso lo leí ayer y se lo vuelvo a leer

la parte vieja es un ejemplo de ese proceso de sobreexplotación mercantil un establecimiento hostelero por cada veintinueve habitantes

doscientos ochenta apartamentos turísticos dos nuevos hoteles en construcción

esto no es gente que se va a tomar un pote esto son camas que están de forma permanente y esa masificación se está dando y si ustedes la niegan evidentemente no van a atajar ese problema y ahora les voy a decir otra cosa

le decíamos en bilbao está empezando a haber un problema a nivel de locales comerciales

y multinacional y ahora les podemos decir que en bilbao está habiendo llamadas de fondos de inversión para comprar al contado pisos en el casco viejo y en bilbao la vieja para dedicarlos al mercado turístico entonces dentro de dos años no nos vamos a llevar las manos a la cabeza diciendo que se está encareciendo de forma brutal como ya está pasando los alquileres en la parte vieja de bilbao y que se está convirtiendo en un parque temático eso es lo que les décimos les pedimos que actúen dicen que no van tarde y les voy a leer

la fuente sobre la tardanza en actuar por parte del gobierno vasco en los pisos turísticos decía ante el elevado número de viviendas turísticas a las que se le ha retirado la licencia en bilbao

el ejercicio de cotejar los datos desde que la ley entró en vigor esto es en septiembre

nadie había cotejado los datos por lo que se había acumulado el trabajo

y nosotros efectivamente estamos comprometidos con la ley de turismo pero creo que aquí quizás la prensa o el ciudadano de a pie pues no diferencia la ley de turismo de la política turística pero la ley genera un marco y ese marco se puede desarrollar en una dirección o en otra porque con la misma ley de turismo se pueden hacer políticas turísticas distintas y ahí es donde tenemos para criticar en el momento en que creamos que las políticas turísticas no están en consonancia con los ejes que está marcando esa ley para poder criticar la política turística sin decir que nos estamos en nuestro apoyo a la ley de turismo que seguimos respaldando sobre el partido popular y su defensa del turismo

de lo que no debe ser el turismo aparte de la innovación esta reciente de los cruceros represivos de meter a los guardias civiles

a aplastar la democracia a barcelona el modelo turístico del partido popular es un contramodelo es el modelo no

y el modelo que describe el modelo de desarrollo turístico del partido popular por ejemplo

ese desarrollismo turístico brutal sin límites que no separa en el reconocimiento a los derechos de las personas y tampoco

el mayor ataque al turismo y no un ataque físico pero en la actitud que mayor daño podía haber causado al turismo en esta comunidad en los últimos tiempos ha sido la actitud

con los que hoy firma esta moción el partido nacionalista vasco y yo por eso le decía se imagina usted señor

las palabras que ha hecho la portavoz del partido popular y que yo le hiciera responder y defender y le acusara precisamente de defender eso porque usted va a votar con ella hoy una moción no sería justo verdad

idoia mendia cuando en agosto reflexionaba sobre lo ocurrido y decía entre otras cosas que nadie puede creer que lo que hacía cinco semanas no era un problema fundamental lo fuesen cinco semanas después tras haber logrado

en este parlamento en el mes de junio y lo más lamentable es que bildu pretende hacer creer que la reacción institucional y política a los hechos ocurridos este verano

es desproporcionado y parece que algunos sienten el aliento de quienes no se sientan en sus escaños de quienes no parecen compartir las decisiones institucionales que bildu toma en todo lo ocurrido hay algo por no decir mucho de ajeno al turismo ajeno a esas cien mil personas que tienen un trabajo en el sector turístico ajeno

gracias a habernos librado de la sombra del terror y gracias a la supuesta

de las empresas del sector turístico son razones más ajenas aun cuando el alcalde de pamplona y el gobierno navarro

del inmenso atractivo que tienen los sanfermines multiplicando por siete la población en apenas nueve días el que fuera alcalde de san sebastián de bildu presumió

a pesar de que durante su mandato proliferaron los pisos turísticos que empezaron a asentarse

sin que se le conociera ningún plan de gestión y ninguna ordenanza para regularlos los socialistas creemos que lo que ocurre es que se añora el famoso que se vayan

deben de tener claro que otros y otras estaremos como estuvimos en el pasado por razones trágicas

y es que los turistas vengan que nos conozcan que sepan qué les podemos ofrecer que se queden más tiempo y que repitan esta experiencia pero no para convertirnos en una tierra de servicios sino para consolidad la turística que es la que nos hace crecer con la enmienda de bildu lo que ha pretendido es dar una muestra más de su incomodidad en este debate de su malestar y de su incoherencia y vuelven a intentar echar una cortina de humo con la excusa de la libertad de expresión dan ustedes la bienvenida a los turistas diciendo que las pintadas y pancartas de turista vete a casa vuestro turismo la miseria de los jóvenes

bola desproporcionada instan el desarrollo de un modelo turístico sostenible como si este nos fuera ajeno a todos los demás partidos políticos cuando el modelo por el que además los socialistas vascos tanto en el gobierno como desde la oposición hemos apostado y es el que ocupa

de turismo siendo un firme defensor del mismo como ayer lo demostró y lo volvió a reiterar instan señoras y señores de bildu a la defensa de una ley

que el consejero asumió desde el minuto cero de su mandato y por cierto una ley aunque se ha dicho que ahora somos saboteadores o que fuimos saboteadores de aquella ley una ley a la que el partido socialista de euskadi euskadiko ezkerra crítico le guste o no señor casanova a bildu le ha faltado una vez más coherencia en el relato

en los argumentos el turismo no es hoy un problema en euskadi como nos decía señor casanova antes del verano y algunos nos ocupamos y nos ocuparemos para que no lo sea en el futuro los socialistas vascos creemos que llegará el día en el que bildu

en algo al progreso de euskadi pero desde luego parece que ese momento no les ha llegado hablaba usted señor casanova de un turismo urbano masificado pues no estamos en esas no estamos y usted lo sabe pero vuelve a intentar hacerse en fin el cubreacciones bildu quiere seguir disfrazando lo que ha acontecido

con que el problema es turístico y no lo es y usted lo vuelve a saber el tema del alquiler y los problemas del alquiler y la subida de precios no es exclusivamente

que se haya obtenido de manera digamos con un análisis matemático sino que es lo que dicen los vecinos de la parte vieja bueno pues no pues no no es el único sitio lamentablemente donde más ha crecido los precios del alquiler en la ciudad de san sebastián se lo puedo asegurar no es el sitio en el que más

sí están marcadas por la ley porque hay veintiuno principios veintiuno que marcan cuál es la política turística que debemos llevar a cabo y que el consejero

debe desarrollar y esas políticas están marcadas y no nos dejamos ni un solo sector turístico si recuerda bien

ni uno por lo tanto yo no sé de qué problema estamos hablando y le voy a decir más

las críticas señora garcía al turismo no han sido solo de este verano

decía usted pero es que este verano se ha cogido como escusa el turismo para hacer actos de sabotaje amenazas coacciones con pintadas con pancartas contra los inmuebles del gobierno vasco a eso nos estamos refiriendo con la enmienda transaccional que hemos presentado partido nacionalista vasco partido popular y el partido socialista y la tasa señora
no es para controlar la tasa no va a controlar nada la tasa lo que hace es recaudar que es lo que pretenden los municipios nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea

establece una serie de no sé de ideas con las que nosotros también estamos de acuerdo

así se lo manifestó pero sí que es verdad que en otros debates y en el de hoy y ayer también yo tengo la sensación de que ustedes se desubican

porque tratan de trasladar a euskadi situaciones que se dan en otras partes de europa y que no tienen nada que ver y los datos

y también una desubicación temporal en el sentido de que yo creo que correctamente y eso lo compartimos usted avisa de lo que puede pasar

el problema es que usted cree que lo que puede pasar ya pasa y eso otra vez los datos no lo corroboran y yo espero que bueno pues de cara al futuro

y con cierta tranquilidad y con cierta racionalidad pues podamos no sé desarrollar políticas en común o acuerdos

en mi opinión yo veo que es posible yo veo que es posible guk onartzen ditugu arazoak reconocemos los problemas en la medida en que

pero es que hablando así incluso el propio reconocimiento viene de la propia ley entonces esto no obvia que se trata de un fenómeno que ha ido a una velocidad exponencial y que se ha desarrollado muy rápido y además le quiero decir otra cosa

sino que hay muchísimas y muchísimas ciudades en europa que lo están haciendo por tanto no es un fenómeno

sino que es global occidental o por lo menos europeo y por tanto existe un reconocimiento claro del problema dentro de dos años que con las medidas que se están adoptando que están en curso yo creo que este problema se haya controlado en buena medida y creo que las previsiones que por ejemplo los alcaldes y concretamente el alcalde de donosti eneko goia nos ha señalado yo creo que bueno que nos dan a nosotros un margen de confianza un margen de confianza

yo no digo que ustedes sean responsables de haber hecho las pintadas de haber parado ridículamente el

de no haber convencido ni controlado ernai pero usted

y sortu está en una coalición que se llama eh bildu pero si ustedes porque no son si no son responsables

si ustedes no son responsables por qué se responsabilizan y porque organizan una reunión

con la portavoz de eh bildu en el parlamento y el entonces secretario general de sortu con los hosteleros guipuzcoanos si ustedes no sois responsables por qué se responsabilizan entonces y por qué se reúnen con ernai para decirles una serie de cosas bueno nik

mirando al futuro hay yo creo que un consenso bastante amplio en esta cámara para decir

un turismo sostenible que sea ordenado equilibrado de calidad respetuoso con el medio ambiente con nuestro modo de vida y nuestra cultura identidad como resultado además

y los amplios consensos que se deben de dar en esas instituciones entre partidos políticos e instituciones yo creo que ese es el camino

camino hecho y debemos retomarlo insisto

de que lo que ha ocurrido en agosto no se vuelva a repetir eskerrik asko